señor uribe etxebarria nos acusa de electoralismo e incluso de hipócritas

electoralismo cuando llevamos todo el año pasado todo dos mil catorce y dos mil quince

en todas aquellas cuestiones que consideramos que se están haciendo mal en el ente e i te be porque esto lo que hoy viene aquí lo del ere

no es más que un elemento más de una mala gestión reiterada

en esta cámara no es más que un elemento más es un elemento que tiene que ver en un contexto más general que tiene que ver con la línea editorial que responde exclusivamente a los intereses del pnv de su gobierno y del nacionalismo

que no responde al esfuerzo que hacen todas las familias vascas para sostener el ente radio televisión vasco no

con cincuenta euros al año para sostener este

de radio televisión un presupuesto un presupuesto el que aporta a la ciudadanía vasca similar

ese es uno de los elementos el elemento fundamental y esto

ni hace una semana esto lo hemos dicho hace varios meses hace varios meses esto lo que hoy está aquí es el reflejo de la incapacidad a parte del mala gestión de la incapacidad de la dirección para llegar a acuerdos estables con

con quienes le apoyamos en una primera instancia no lo ha hecho con los que los han apoyado coyunturalmente

porque señor uribe etxebarria no me diga usted que llegó a acuerdo

una situación de conflicto más grande en el ente radio televisión vasca que la suscitada a través de esto cuántas veces se ha visto que se enmudezcan las emisoras

esto era el acuerdo al que había llegado la dirección con los trabajadores

esa es la cuestión de fondo esa es la cuestión que venimos aquí el ere por supuesto

pero es el conjunto de la gestión de la mala gestión que ha hecho esta dirección lo que nos ha llevado a esta situación y lo que nosotros insisto

denunciando insistiendo y tratando de corregir desde hace más de un año desde hace más de un año y usted señor uribe etxebarria nos dice que en el mandato del señor surio

del ente no se hizo nada primero hay que partir de cómo surge el problema este problema que hay sobre la mesa de los indefinidos no fijos

no aplicando la ley de creación del ente radio televisión

y contrata a cien personas básicamente de dos maneras haciendo unos procesos

sino a un procedimiento de incorporación al ente a través de ciertas pruebas y a otros de una forma mucho más directa con un contrato mercantil

en que se trasgrede la ley por parte del señor ortuzar y por parte de aquella dirección el señor surio usted y yo sabemos y todos lo sabemos que intentó solucionarlo

había acuerdo con los trabajadores que no se llegó a acuerdo con los trabajadores y entonces como se considera y seguimos considerando que un asunto de estos un ere

en este caso se ha hecho sin el consenso de los trabajadores y si no lo hizo la regularización de aquel problema que había

no lo regularizó el señor surio fue porque no tenía el acuerdo con los trabajadores porque no tenía el acuerdo con los trabajadores simple y llanamente y yo simplemente decirle que efectivamente nosotros nos abstuvimos pero ya le he dado las razones y nosotros hicimos una serie cuando se plantea esta

de cuestiones que debían haber sido abordadas como el estudio en general de la plantilla como las implicaciones jurídicas que tenían y no se nos hizo ningún caso y efectivamente al minuto dos consideramos que aquello

una vía incorrecta para solucionar un problema que ustedes mismos había generado eskerrik asko unzalu jauna

gracias bien antes de nada sí solicitar la enmienda de transacción se pueda votar por puntos porque aquí señor unzalu lo importante lo fundamental

que el ere se paralice y que haya una responsabilidad por la gestión y no una utilización política hablando de la reforma laboral porque por eso nosotros aquí a pesar de pedir

en muchísimas ocasiones por la dirección ideológica que tiene esa casa porque como hemos dicho nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones es una televisión

no puede ser pero aquí nos vamos a centrar en lo que es el asunto que nos ha traído aquí que es el tema del ere y nosotros

del error que habían cometido y han intentado según ustedes enmendarlo desde entonces pero nosotros desde el minuto uno votamos en contra

donde se produjo todo ahí y donde se podía haber impedido

ahí pero los representantes de bildu votaron a favor

a cambio de qué cuál era el acuerdo al que ustedes habían llegado explíquenlo porque ustedes

que setenta y nueve trabajadores se vayan a la calle y que se reduzca la plantilla

no no ustedes lo asumieron y dieron el voto a favor a cambio de qué qué les ofrecieron y qué no les han dado o no han cumplido para que lo que entonces valía ahora ya no valga porque se amortizaron treinta plazas en esa decisión se amortizaban treinta plazas era así de claro y setenta y nueve personas se iban a la calle con la excusa

de que lo que demanda la sociedad es una radio televisión multimedia avanzada y bilingüe no sabemos si lo del bilingüe es de verdad una reclamación de la sociedad o es un deseo político fundamentalmente suyo y también del partido nacionalista vasco teniendo en cuenta que la sociedad

que los de euskera y mire señor uribe etxebarria de verdad es insoportable la retórica victimista del partido nacionalista vasco es

ustedes siempre están en el justo término medio y todos los demás estamos equivocados y es insoportable esa arrogancia de la que usted

atribuyendo la justificación de las decisiones que tomamos en el consejo de administración votamos que no y votamos que

claro que a setenta y nueve personas se las iba a echar a la calle y que iba haber treinta plazas menos en e i te be

la alusión a otras televisiones ya me imagino pero miren es que se lo he dicho antes

y hay que asumir las consecuencias de esas decisiones y no ir a lo más fácil y lo más fácil era echar a estas setenta y nueve personas y hacerles

quién ha gestionado la televisión pública quién porque ustedes ahora en echar balones fuera son expertos pero quién ha gestionado la televisión pública quién es el responsable quién no cumplió las normas de acceso al ente y ha permitido que haya personas que estén transitoriamente treinta años

porque vamos parece que ustedes pasaban por allí parece que pasaban por allí ustedes no hacen ninguna autocrítica ninguna todo lo que han hecho lo han hecho bien

que dio no fue un ataque al autogobierno la directora no al revés dijo que es que no tenía sentido el recurso porque si se iba a disminuir la plantilla de e i te be si con la ope lo que se iba a hacer es que en lugar de haber más empleados iba haber menos pero vamos

pues mire le voy a decir etb

desde la llegada de la señora iturbe vive el peor momento de su historia

con índices de audiencia como las que tiene con redacciones empapeladas con denuncias con una gestión laboral a todas luces

con siete días de apagón informativo cuándo se ha vivido eso en el ente y esa resposabilidad de este gobierno y de esta dirección

y era su responsabilidad era su gestión y lo han hecho de forma

nefasta y el tiempo nos ha dado la razón lo que decíamos desde el principio lo que decían desde el principio los trabajadores esto
era y es un ere nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

hori ez da gure eredua en el año dos mil tres sobrevino una situación producto también de una sentencia y de un cambio en el panorama laboral y entonces se pasaron toda una serie de contratos de obra a mercantiles

consenso del gobierno vasco del consejo de administración de los sindicatos de este parlamento y voy a volver a repetir lo que en aquella ocasión los distintos portavoces alguno de los cuales está aquí como la señora celaá que no sé si lo recordará treinta de diciembre del año dos mil tres luego se lo recuerdo no se preocupe dijeron y entonces la señora

que nadie puso en cuestión en los siguientes cinco seis siete años

nadie puso en cuestión ahora es muy fácil hablar de irregularidades

quiero agradecer las explicaciones del señor ortuzar punto y se acabó por cierto el señor surio

el del recurso dice no hay cuestión quiero agradecer las explicaciones del director general que por otra parte ya conocíamos a través del consejo de administración

totalmente de acuerdo baina jon salaberria garai horretan euskal herritarrokeko

mesedez vamos a ver ustedes tuvieron responsabilidades en e i te be señor

el paso de los mercantiles a los no fijos indefinidos no fijos se produjo en su mandato ustedes lo pensaron lo estudiaron hicieron algo me puede confirmar que hasta las más altas instancias del gobierno

como además responsable de administraciones públicas todo eso se abordó se estudió por qué no se hizo no ustedes pegaron la patada para delante

ustedes están en una estrategia de la confrontación del acoso y derribo y es una postura

han salido como los opositores más acérrimos a todo este proceso conflicto

eso sí que es conflicto conflicto profesional partido popular señora llanos no se han mostrado ustedes en contra de la cpe por defender los derechos de los trabajadores no señora no

y en manifestaciones que han hecho ustedes les encantaría un ere pero a lo bestia y dejar e i te be en la mitad o en un cuarto de lo que es eso es lo que les gustaría en serio y privatizar todas las televisiones autonómicas y efectivamente no me voy a referir a todo lo que han hecho en valencia en madrid en castilla

la mancha pues porque no tengo tiempo pero usted sabe que no es desde luego una hoja de servicios suficientemente presentable como para avalar ideas en cuanto a la gestión de una radio televisión pública la plantilla estructural es

y eso lo fija el parlamento y actualmente sigue siendo y con esta cpe

que es lo que tiene que tener aitzakiak besterik uste dut aurkitzen joan zaretela

bera puertorrikarra bilbon guardia zibilak

con total firmeza los controles que todavía a día de hoy realiza la guardia civil y la policía española en este país el primero por ese pasado maldito que acompaña a los controles en reconocimiento a las víctimas que generaron

que aquello que sucedió nunca más volverá a acontecer ante el riesgo real más que real de que siga sucediendo

con profusión de armamento de guerra con sus pertrechos militares y su prepotencia mantiene vivo el agravio

sin disculpa en la que poder cobijarse eta no puede servir de excusa para estas intervenciones después de tres años y medio que abandonó

controles contra eta sin eta controles sin ningún motivo

ni objetivo constatable si no es la de mantener la coerción la coacción esa imagen

tan del agrado de algunos de territorio ocupado que se traslada por medio de los controles militares

el segundo de los motivos es porque esos controles vulneran derechos de la ciudadanía esos controles no tienen un objetivo preventivo de seguridad

en persecución de quienes presuntamente hayan perpetrado nada de hecho no persiguen a nada en concreto ni persiguen evitar o eludir delitos no persigue a nadie individualizado

a toda la sociedad vasca sospechosa toda la ciudadanía vasca objetivo posible de persecución todos y todas presuntos culpables prácticas injustificadas absurdas que únicamente trasladan una sensación de autoritarismo y prepotencia

operativos que hemos podido ver estas últimas semanas no más que una obscena propaganda

su eficacia es nula si no es para restringir aún más los derechos

si no es para propiciar un espacio para la agresión verbal física

para incautarse de cualquier cosa de cualquier propiedad

de cualquier otra índole para atacar al derecho de la persona a su vida privada y a su honor al someterle a un clima de acoso injustificado una situación de hostigamiento y absoluto

tercero y último porque estos controles suponen una invasión competencial porque no tiene una habilitación legal para poder llevarse a la práctica cierto pero sin duda el menos revelante de los argumentos es un argumento legalista

que es precisamente el que parece haber invocado el pse y el pnv en sus enmiendas obviando cualquier otro diría que el pse incluso iba un poco más allá porque en su primera enmienda a la totalidad hablaba de disfunciones algo que incluso desaparece

de la enmienda transaccional ez naiz luzatuko

bultzatu gintuen ekimen hau aurkeztera fórmulas viejas para realidades nuevas decía aseguraba que estos controles siguen produciendo molestias afectación a personas e incluso aversión decía que los ciudadanos tienen derecho a expresar ese malestar y esa molestia ciudadanos y ciudadanas

palabras de la consejera y eso era precisamente lo que hoy queríamos traer por medio de esta iniciativa atender percepción ciudadana trasladar esa sensibilidad trasladar esa sensación a esta cámara y era cierto que apenas nos hubiese valido cualquiera de las expresiones realizadas por la señora consejera molestias

malestar aversión pero nada de esto encontramos en la propuesta que pnv y pse han transado

y es por eso que no la apoyaremos seguritatearen izenean dena justifikatuta omen dago batez ere

sí gracias presidenta en fin al señor

no le preocupa el paro no le preocupa la precariedad laboral ni la desigualdad ni los desahucios

ni tampoco la corrupción política al señor arzuaga tampoco le preocupa

ni antes ni su disolución ni que entregue las armas

ni el narcotráfico ni el terrorismo internacional algunos de los asuntos que pretenden hacer frente los controles policiales

le preocupan los propios controles policiales y en concreto y para decirlo con mayor rigor

lo que le preocupa es la policía nacional y la guardia civil en conclusión al señor

aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que luchan contra los delincuentes

nunca le preocupó eta ni los asesinatos cometidos por la banda terrorista eta al señor arzuaga lo que siempre le preocupó fue

de controles policiales para luchar y detener a los delincuentes y a partir de esa absurda exposición de motivos

o supuestas desventajas de poner en marcha por parte de la policía nacional y de la guardia civil controles policiales habla de muertes habla de accidentes habla de vulneraciones de derechos humanos habla de abusos habla de incomodidades habla de molestias hombre incomodidades y molestias sí

absurda falacia una gran mentira un cúmulo de falsedades los controles que llevan a cabo la policía nacional la guardia civil y la ertzaintza son indispensables luchar contra los delincuentes y a partir de ese argumentario facilitado por cierto en parte por la señora consejera que ahora no está lo que propone suprimirlos sobre todo por los controles que lleva a cabo la policía nacional y la guardia civil aunque también señala copiando a la consejera que por la forma e intensidad con las que se producen esos controles y puestos en marcha por la policía nacional

cómo deben realizar los controles policiales la policía nacional y la guardia civil

y de la policía nacional para el montaje y sobre todo desmontaje de los controles policiales en carretera

si el responsable último de perseguir a los delincuentes fuera

creo que nos íbamos a echar a temblar todos los ciudadanos pacíficos y decentes de euskadi

ciertos conocimientos en relación a determinados modos pero la verdad es que prefiero dejar este asunto en manos de profesionales y en manos también

de la policía nacional y de la guardia civil pero el problema en mi opinión no es tanto lo que venga a decir aquí o a plantear

pretende que la policía nacional y la guardia civil se vayan de euskadi ya sabemos cuál ha sido su trayectoria el problema aquí en mi opinión es quién

debate y la respuesta es evidente quién impulsó este asunto quién cuestionó la puesta en marcha de esos controles policiales es sencilla

consejera de seguridad del gobierno vasco quien de modo absolutamente irresponsable y gratuito en fin impulsó esta polémica

recogen por lo tanto el guante los hermanos brutos del nacionalismo para

seguir desprestigiando o intentando desprestigiar a la policía nacional y la guardia civil qué es lo que dijo la consejera de seguridad y sobre todo dónde

consejera de seguridad dijo que existe un enfado entre la ciudadanía vasca a causa de los controles que instala la guardia civil en euskadi por las molestias generan a ustedes les parece esto serio que esto lo traslade la propia consejera de seguridad pero no que lo traslade en la junta de seguridad correspondiente no que se lo haga ver o que lo pueda plantear al ministerio sino que lo haga en una entrevista radiofónica

en nuestra opinión lo censurable que la consejera de seguridad en una radio plantee que los controles de la policía nacional o de la guardia civil son absolutamente innecesarios están puestos mal en marcha y únicamente provocan molestias

esto es lo grave que lo diga la propia consejera de seguridad y que además lo diga en una radio de manera absolutamente gratuita creo que por hacer méritos me imagino entre la parroquia nosotros le preguntamos acerca de esta cuestión a la propia consejera y dijo

consideramos que determinados controles de la guardia civil y de la policía nacional

tal y como se están realizando a día de hoy en la forma y manera en la que están realizando no tienen justificación suficiente desde el punto de vista de la seguridad operativa que presuntamente persiguen esto es lo que dijo la consejera de seguridad y nosotros se lo dijimos por qué no hace la llamada correspondiente

sobre esta cuestión por qué no se convoca a la junta de seguridad para que puedan debatir sobre esta cuestión allí por qué es más se negó usted

había convocado es muy sencillo porque la consejera de seguridad no quería resolver ningún supuesto problema sino que lo que creía conveniente era crear polémica ganar puntos entre la parroquia

a la policía nacional y la guardia civil y yo le decía a la propia consejera en un pleno de control ha puesto en duda y ha atacado la profesionalidad de la guardia civil y lo ha hecho de manera irresponsable ese ha sido su último objetivo hacer propaganda

a la consejera de seguridad no tiene su teléfono por qué actúa de esa manera tan irresponsable por qué lo expresa de ese modo por qué no habla con el ministro para explicarle todo esto porque lo que pretende es hacer propaganda

un problema o un supuesto problema sino que lo que a usted le preocupa es desprestigiar a la policía nacional y a la guardia civil y porque quiere

más radical y porque seguramente buscaría el aplauso de los más radicales

por propios complejos en fin por lo tanto

en nuestra opinión no tiene mayor relevancia que eh bildu venga a proponernos esto ahora va a ser rechazada su iniciativa

fue la propia consejera quién impulsó este debate de manera gratuita la consejera lanza la piedra esconde la mano

eh bildu plantea una iniciativa donde algunos de los argumentos planteados por la propia consejera y finalmente el grupo nacionalistas vascos firma con el grupo socialista una transaccional

y todo esto para qué a nosotros nos parece una enorme

por cierto el grupo socialista que efectivamente presenta una enmienda que incluso iba más allá que la propia enmienda planteada por el grupo nacionalistas vascos

plantea que este parlamento considere que los controles que se efectúen por los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado deben basarse en el respeto al sistema competencial establecido en la constitución y el estatuto de autonomía

deben igualmente guardar la adecuada proporcionalidad entre los objetivos de seguridad perseguidos y los medios adoptados

con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la vida de la ciudadanía y yo quiero preguntar al grupo socialista

o algún tipo de información que le haga decir que esto no está siendo así o si finalmente simplemente confía y da credibilidad

planteadas por la propia consejera en fin da credibilidad

dan ustedes credibilidad a lo que planteó la señora consejera tienen ustedes informes estudios que vengan a decir que efectivamente eso controles no se están llevando a cabo correctamente datos tienen y a pesar de que ustedes han firmado una transaccional que nosotros vamos a rechazar en fin yo creo que esas preguntas se mantienen y ustedes pueden si quieren

gracias señora presidenta señorías les confesaré que después de oír la intolerable

porque no se pueden hacer acusaciones tan graves sin que estén avaladas y usted hace acusaciones terribles en contra de la guardia civil y la policía nacional que no están avaladas pero

hacer la intervención que tenía prevista porque no hay mayor desprecio ante actuaciones tan irresponsables como la suya que pasar de ellas o pasar lo más rápidamente de ellas y comenzaré mi intervención

a los socialistas vascos nunca nos ha sobrado no nos sobra

la presencia de la policía nacional y de la guardia civil en euskadi primero porque tienen asignadas competencias en nuestras leyes que les obliga a cumplir con sus responsabilidades también en euskadi pero segundo porque la policía y la guardia civil tienen nuestro máximo respeto nuestra máxima consideración y agradecimiento por la tarea

en euskadi en circunstancias muy difíciles porque han luchado en primera línea contra el terrorismo hasta su desaparición han defendido la democracia

las libertades y el estado de derecho los agentes de la policía nacional y de la guardia civil han tenido que soportar de forma injusta ataques insultos aislamiento social por una gran parte de la sociedad vasca

con la vida de los agentes de los muchos agentes que han sido asesinados por cumplir

las libertades la democracia y el estado de derecho en esta tierra y tenemos la obligación de reconocer ese trabajo y de decir también una vez más

haber velado por nuestra seguridad haber impedido que nos asesinaran por eso no vamos a contribuir a esa campaña

en la que se plantea que se vayan porque simplemente no estamos de acuerdo nosotros insisto queremos que la policía y la guardia civil

en las leyes que son luchar contra el terrorismo sea cual sea su signo las vigilancias de puertos aeropuertos costas fronteras control de entradas y salidas pasaportes dni

pero dicho esto con la misma claridad también décimos que una vez más defendemos

y que el gobierno de españa no puede como es en el caso en que estamos discutiendo mantener una proliferación de controles

que a nuestro juicio no se justifican ni en intensidad

y menos en la situación en la que estamos viviendo ahora y esto no es nuevo es verdad que se lo hemos dicho al gobierno de españa cuando

así se lo comunicamos al ministerio para decirle que había que abordar estas y otras cuestiones en las que desde nuestro punto de vista podía estar invadiéndose las competencias de la ertzaintza como policía integral

por eso y en coherencia con lo que hemos hecho cuando gobernábamos hoy también mantenemos una iniciativa que después se hacer transformado en una enmienda transaccional que pide cosas absolutamente razonables primero

la policía la guardia civil la ertzaintza y las policías locales se atengan y desarrollen su trabajo con estricto cumplimiento a las competencias que tienen asignadas

que atendiendo el nuevo tiempo que vivimos los controles en carretera se adecuen en frecuencia e intensidad para conseguir dos cosas que son fundamentales uno

la normalidad de la vida ciudadana cuando se pueda garantizar la seguridad y tercero que como queremos que estas cuestiones se resuelvan

político o la confrontación que se convoque lo antes posible la junta de seguridad para poder abordar estas cuestiones y buscar soluciones para que

de la guardia civil la policía nacional y la ertzaintza especialmente también cuando sea necesario las policías locales reitero cada uno

por eso pido a la cámara que tenga en cuenta el contenido de la enmienda transaccional las explicaciones que estamos dando y no
algunos de los debates que se están planteando en esta cámara que tienen poco que ver con esta iniciativa eskerrik asko

inongo arrazoirik es evidente señorías que el número y la operativa de los numerosos controles que principalmente la guardia civil

no están justificados ni responden a las competencias que tienen legalmente reconocidas y por supuesto que las molestias que crean en la ciudadanía no son proporcionadas a los objetivos que presuntamente persiguen diez controles diarios con la situación de seguridad que hay en euskadi por parte de la guardia civil es un evidente exceso y a todas luces más evidente si se compara con que es el número de controles paliativos de esa forma o intensidad

viene a poner en un año todo ello por tanto justifica la enmienda que sometemos a la consideración de este pleno una enmienda que se baja en el respeto escrupuloso a la legalidad al reparto competencial establecido

euskadi es un país seguro con una calificación de diez sobre diez

y con un ratio de policías por habitante muy superior no hay ninguna razón que justifique el mantenimiento del número de efectivos

que hay en euskadi ni de los controles de carreteras que establecen ninguna

la que pudiera existir dejó de hacerlo hace ya más de tres años sin embargo el gobierno español se niega a atender la realidad se niega a cumplir la ley

en este tema el gobierno español se ha convertido en un gobierno insumiso insumiso a la ley que dice defender con más ímpetu que nadie

de negarse a convocar la junta de seguridad tal y como ha solicitado reiteradamente la consejera de seguridad y este mismo parlamento hace ya casi ocho meses es imposible señor maneiro material y metafísicamente imposible que la consejera le diga nada al ministro del interior en la junta de seguridad porque este se niega a convocarla bien pues a pesar de esta insumisión a pesar de las descortesías de la falta de compromiso

no cejamos ni cejaremos en el empeño y por eso volveremos a votar hoy por el respeto a la ley por el respeto al estatuto de autonomía

como policía integral y por el respeto institucional entre gobiernos y en contra de la insumisión
del ministro del interior y del gobierno central nada más gracias eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta y ahora ya buenas tardes casi mire yo traía aquí una intervención

la voy a poner de manifiesto y una de las primeras cuestiones que iba a plantear es que esta propuesta

un claro trasfondo político pero no es que tenga trasfondo político es que aunque

discursos como el que ha hecho los hace a menudo en esta cámara lo que no se puede consentir es que precisamente porque ya es habitual que los haga en esta cámara dejar pasar la gravedad de lo que usted ha dicho aquí es absolutamente

el discurso que usted ha hecho hoy aquí indignante además de exagerado es indignante ha leído una serie de nombres

de una serie de personas y yo le reto a una cosa lea los casi

de los asesinados por eta y condene su asesinato porque mire si hay responsabilidades en muertes que usted aquí ha relatado nosotros somos los primeros que décimos que esa responsabilidades

la responsable era eta pues usted aquí hoy condene a eta y debo decirle

que lo primero que nos llama la atención claro que en eso la señora consejera ya se lo puso en bandeja

en la réplica porque a ustedes igual que a ella y al partido nacionalista vasco no le preocupan los controles

es lo único que le preocupa lo único porque la realización de los controles policiales

dos cuerpos policiales se ajustan perfectamente a derecho y encajan

y nosotros desde este grupo siempre hemos apostado por la colaboración entre los cuerpos policiales por aprovechar las sinergias entre los distintos cuerpos policiales colaboración que debe realizarse siempre poniendo en el punto de mira la colaboración y no utilizando

partidistamente esa colaboración las referencias a la proporcionalidad entre frecuencias medios intensidades se deben realizar por profesionales del medio y nosotros damos fe de que la guardia civil y la policía nacional

de profesionalidad y desde luego aquí decía el señor ares

créanme que yo me fio más de la experiencia y de la profesionalidad de los propios cuerpos policiales

porque estamos convencidos de que la realización de esos controles se ajusta a criterios de proporcionalidad como todas las actuaciones policiales

para denunciar esa falta de proporcionalidad ustedes han construido una burbuja

su iniciativa estaba trufada de exageraciones interesadas hablaban de violencia verbal o física de violaciones de derechos y libertades de violación del derecho a la libre circulación y a la libertad física pero es que ya en su intervención ya

no ha hecho una intervención absolutamente mezquina y absolutamente inaceptable

ustedes han hablado también de pasado maldito de los comandos del gal

del armamento de guerra de la ocupación militar

tomados prácticamente que vivimos en un estado policial

todos los días todos los ciudadanos se están quejando del gran número de controles que hay y de que

no se pueden desarrollar la labores cotidianas con absoluta normalidad por parte de los ciudadanos y además vienen a decir más ustedes que el partido nacionalista

de los ciudadanos ya le digo tratan de deformar la realidad existente

cuando se pregunta a los ciudadanos por sus preocupaciones vamos dado lo que se ha dicho aquí parece que

porque los ciudadanos tienen tantas quejas y están tan sumamente perturbados en su normal actividad diaria

expresarse como una de las principales preocupaciones y no es así porque eso forma fundamentalmente parte de las obsesiones

obsesiones suyas fundamentalmente pero también compartidas por el propio

y son obsesiones no en torno a los controles sino en torno a la guardia civil y a la policía nacional y usted ha hablado señor arzuaga de métodos anticuados y el pasado

incapaces de condenar son ustedes ustedes quienes son incapaces de avanzar porque siguen anclados en el pasado son ustedes quienes

ustedes porque representan el discurso más caduco y más trasnochado de este país y el suyo hoy aquí lamentable los controles son una práctica que se utiliza en todos los países que parece que solamente se realizan en españa y un ejemplo lo ha sido

los controles que la gendarmería francesa realizó en el caso de los asesinatos

tampoco la policía gala en su intento de detener a los culpables realizaron numerosos controles cuál es la diferencia

pues que ningún partido en francia se cuestionó este tipo de actuaciones policiales ninguno

claro pero ustedes no ustedes y algunos otros

la realización de controles es una persecución implacable y en ustedes es que es normal porque justifican siempre a los delincuentes y cargan las tintas contra aquellos que defienden el orden

desde este grupo vamos a defender la práctica policial de los controles porque entendemos que más allá de las molestias que sí que nosotros también reconocemos que pueden causar molestias a las ciudadanía deben ser

y cuáles controles son necesarios porque siempre

que tiendan a combatir el delito y que guarden eso sí una adecuada proporcionalidad con los fines y los medios que utilizados para ello y es que aquí

subyace una vieja cuestión que es histórica para el nacionalismo la propia consejera

pero esto no es más que una excusa es una excusa para volver a poner sobre la mesa lo que durante tanto tiempo hemos escuchado

alde hemendik el fuera de aquí hoy son los controles pues mañana será otra cosa pero es lo mismo señor iturrate siempre

y nosotros siempre nos vamos a oponer a cualquier iniciativa en este sentido nosotros no vamos a tolerar que se manche como se ha hecho hoy aquí por parte del señor arzuaga ni el nombre de la policía ni el buen nombre

porque hay quien en este país ha vulnerado sistemáticamente los derechos

de ustedes y otros entre ellos la ertzaintza

y la policía nacional lo que han hecho precisamente es salvaguardar esos derechos y libertades y es evidente que no es imposible llegar a un acuerdo con ustedes porque no hablamos el mismo idioma estamos

mientras para nosotros los cuerpos policiales en su conjunto son un elemento fundamental del estado de derecho y un garante de los derechos y libertades

porque mientras para ustedes las diferentes policías como le digo solo sirven para vulnerar derechos y no para protegerlos difícilmente

porque mientras ustedes sigan invirtiendo el papel entre los que defienden la ley

desde luego nuestra capacidad de interlocución es nula absolutamente nula
y existen una serie de premisas que son básicas en cualquier sociedad llanos andrea amaitzen joan sí voy acabando señora

como los defensores de nuestra libertad y de nuestra seguridad sin el reconocimiento

ustedes y nosotros interlocución nula eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz

maneiro jaunak nos dice que preocupa no preocupa lo que yo traigo o dejo de traer a esta cámara sin embargo

que hizo una interpelación con la consejera que lo trajo a un pleno de control por lo tanto algún tipo de interés también tendrá al respecto y me dice también que mis afirmaciones están basadas en la falsedad la mentira la falacia la demagogia

la existencia de víctimas mortales

en estas prácticas de controles en carretera tal vez como usted dice en su enmienda

policía nacional en todo caso serán actos de reconocimiento que podrán hacer una vez hayan desaparecido de nuestras calles de nuestras carreteras de nuestros pueblos porque este es el camino al que están abocados señor ares me decía que no estaban avaladas las afirmaciones que yo he realizado

y le tengo que decir que no sé si serán graves acusaciones pero

vienen también avaladas por esa comisión de valoración del decreto de vulneraciones de víctimas por motivación política que usted se jacta de ser

por lo tanto es cierto que tienen poco aval

intentemos trabajar más en profundidad para avalarlas y para darles el reconocimiento la reparación que merecen y también que ese es el elemento que hoy traemos a este debate la garantía de que lo que sufrieron nunca más ningún otro lo volverá a sufrir y a padecer

markatzen du proportzionalitatea non dagoen nork zehazten du proportzionalitate hori porque le hace usted una interpelación precisamente al

para que sea él quien interceda en esta cuestión nork zehazten du proportzionalitatea barne ministroak

cierto estamos en el que se vaya alde hemendik

sin embargo no era esa la propuesta tampoco que traíamos aquí me dice usted señora llanos que deformo la realidad la realidad

al año ciento cincuenta mil controles de carretera

en los últimos cincuenta años quinientos millónes al año en fuerzas y cuerpos de seguridad del estado si se prefiere dar la dimensión de otra manera diferente hitz egiten diguzu iraganaz estamos incapaces de avanzar

sí gracias presidenta no señor arzuaga me ha entendido usted mal yo le planteé

aquella iniciativa parlamentaria a la señora consejera no porque me preocuparan los controles de la policía nacional y de la guardia civil sino porque me preocupaban

declaraciones en una radio en relación a esos controles a mí los controles que pueda realizar la policía nacional y la guardia civil no me preocupan en absoluto y no creo que sean en absoluto un problema fundamental de la sociedad vasca ha venido aquí a plantear y esa es la pena que como consecuencia de una serie de declaraciones que no venían a cuento de la propia consejera de seguridad

perdiendo el tiempo debatiendo asuntos que solo interesan al mundo de la izquierda

que este parlamento en lugar de resolver los problemas fundamentales que tienen los ciudadanos y que tiene la sociedad tiene que volver a debatir cuestiones

interesan a eh bildu y que tienen como único propósito no mejorar la vida de nadie sino perjudicar denigrar desprestigiar a la policía nacional y a la guardia civil

y yo sospechaba efectivamente que aquellas declaraciones iban a tener consecuencias y las consecuencias son estas

lanzado por la propia consejera de seguridad cuando realizó aquellas afirmaciones efectivamente las soflamas y las afirmaciones gravísimas realizadas por el señor

evidentemente pero es que fue la consejera la que

y la señora llanos ha dicho expresamente se lo pone en bandeja se lo puso en bandeja a que el representante de eh bildu presente

e incluya en su propia justificación alguno de los argumentos planteados por la propia consejera esa es la pena que estemos otra vez debatiendo de temas que solo interesan a eh bildu y que tienen ese objetivo desprestigiar en última instancia a la policía nacional

y creo que ustedes el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi no tenían que haber entrado en su juego de cuestionar los controles de la policía nacional

político del que alguno hablaba ya es un hecho y ya digo lo impulsó la propia consejera de seguridad y ustedes de manera más medida ciertamente lo mantiene vivo en su enmienda de transacción no tenían que haber entrado por lo tanto en su juego político porque además se sabe perfectamente que la idea y el propósito de eh bildu no es mejorar esos controles no es mejorar la seguridad de los ciudadanos no es atender

sino montar lío montar lío y desprestigiar

mi enmienda en la que proponemos que este parlamento defienda y agradezca la labor realizada por la guardia civil y la policía nacional en euskadi que rechace la recientes críticas vertidas por la consejera de seguridad en relación a los controles que ambos cuerpos

y que inste al propio departamento y al gobierno a que cualquier discrepancia preocupación o queja la pueda realizar en la correspondiente junta creo que en eso se tendría que haber basado una transaccional apoyo a la policía nacional y a la guardia civil cualquier discrepancia cualquier problema que se debata internamente en la junta de seguridad que desde luego

upyd esto es lo que yo creo que se tenía que haber hecho creo que esta era la manera más apropiada de responder a las soflamas de eh bildu

y a la policía nacional decía el señor iturrate que votaremos a favor del respeto a la ley que votaremos a favor del respeto al estatuto

y respeto a la lealtad institucional perfectamente

y lógicamente en fin lo respetamos pero también podían haber votado y pueden votar a favor de la policía nacional y de la guardia civil

no por nada porque justo eh bildu pretende lo contrario y puesto que

hubiera estado muy bien que el resto de partidos políticos hubiéramos pactado una transaccional para defender a la policía nacional y a la guardia civil

la guardia civil y la policía nacional no van a desaparecer de nuestras calles

presentes entre nosotros porque son indispensables

reconoce que no le importa mentir en base a informaciones que no están contrastadas para sostener sus argumentos

ha citado hay que contrastarlos y me emplaza a ver si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para contrastarlos sí pero demuestra

que no están contrastados y usted me remito a su intervención ya los da como claros porque nada menos que ha acusado a la guardia civil y la policía nacional de asesinarlos y eso pone de manifiesto

su catadura moral y su falta de ética una vez más pone de manifiesto que están dispuestos a usar todo para sostener sus campañas

y todo no vale en democracia todo no vale en democracia hay que tener un poco de rigor

y veracidad en lo que uno dice y hace y una vez más se pone de manifiesto que rigor

y a una parte de los compañeros de su grupo mire usted

que hay que tratarlo con rigor y nosotros hemos intentado señor maneiro señora llanos tratarlo con rigor a pesar de esa

intervención y por mucho que se empeñen estoy seguro que ni la guardia civil ni la policía nacional se van a ir

y lo que reclamamos algunos es que las cumplan estrictamente en aquellas que tienen asignadas que es lo que nos diferencia con ustedes porque señora llanos

no es que los señores de eh bildu no quieran controles de la guardia civil ni de la policía nacional

no quieren controles ese es lo que diferencia a los que defendemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tienen una tarea fundamental para defender las libertades

y los que les gustaría acampar a sus anchas como han pretendido siempre a lo largo de su historia eso es

no debemos equivocarnos señor maneiro

la enmienda transaccional con detalle porque dice

que cada cuerpo de policía guardia civil o ertzaina u otras policías se atengan estrictamente a sus competencias que coordinen sus actuaciones

la seguridad de toda la ciudadanía pero que esa garantía de seguridad tiene que hacerse siempre con proporcionalidad ajustada a las necesidades en cada momento y eso es lo que pretendemos que se haga en la junta de seguridad

resuelva los problemas donde tienen que resolverse que es en la junta de seguridad eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

beraz ez iezadazu tranparik egin debate honetan yo ya sabía que esto iba a pasar que si algunos iba a cantar

aquellos que dicen estar en contra de que se vayan pero siempre acaba usted cantando esa canción señora llanos yo lo que creo que a usted lo que realmente le gustaría cantar es la famosa zarzuela del niño judío y que es lo que está detrás de toda

y mi cara serrana lo va diciendo he nacido en españa soy español y

que les hace posicionarse siempre cerrando y apretando las filas detrás de la guardia civil y de la policía nacional y no entender y no aceptar

la policía integral de este país mire efectivamente claro que en francia se pusieron controles

pero es que en euskadi en los últimos años no ha habido ningún atentado de ningún tipo y mire lo decía la consejera en el pleno de control lo dijo y hoy voy a traer yo la muestra gráfica de aquello que dijo mire tecleen ustedes en internet controles de la guardia civil en españa y les saldrá esto esto es un control de la guardia civil en españa y tecleen controles de la guardia civil en euskadi y les saldrá esto

es comparable si los modos la proporción de números de armamento

es justificable está justificado pues no hace falta el señor iturrate no será el más listo de esta cámara no llegará quizá tampoco a su altura

que esto no tiene justificación que esto no tiene nada que ver con las competencias que tiene tasadas la guardia civil y la policía nacional en el estatuto de autonomía puertos aeropuertos inmigración fronteras sobre todo cuando ponen los otros controles si los pusieran en el puente de biriatou pues todavía

no hace falta ser experto en seguridad para saber que eso es una desproporción absoluta

ustedes se oponen a la ertzaintza como policía integral de este país por eso es usted militante de un partido político

se mantiene insumiso al estatuto de autonomía se mantiene insumiso y mantiene aquí un ratio policial de seis coma nueve que triplica duplica en el menor de los casos los ratios de policía de cualquier país de la unión europea mire cuando el señor mayor oreja era ministro del interior hace ya unos años afortunadamente dijo

condicionado a la desaparición de eta y decía en una respuesta parlamentaria

ello motiva que se realice un reajuste continuo de plantillas en el que entre otros factores se tiene en cuenta la conflictividad social y determinadas formas graves de delincuencia entre ellas al terrorismo una vez que este desaparezca hace ya unos años

se tendrá en consideración este reajuste están ustedes de acuerdo con esto

creen ustedes que la guardia civil la policía nacional tiene que estar aquí para las competencias que el estatuto y la constitución les asigna pues hagan lo que tienen que hacer primero convoquen la junta de seguridad díganle al ministro de interior que convoque la junta de seguridad que deje

con el gobierno vasco que convoque la junta de seguridad y que proceda a la adecuación de la policía nacional y la guardia civil en euskadi y que se atenga a unos ratios normales normalizados de policía por habitante y que lleve las actuaciones de la guardia civil iturrate jauna amaitzen joan por caminos de racionalidad y no de desproporción como las que nos tiene acostumbrados nada más

que usted no deformaba la realidad no es que vive en una realidad deformada no es que deforme la realidad vive en una realidad deformada porque usted habla

de pasado maldito de ocupación militar de verdad o sea aparte de ser un lenguaje absolutamente caduco

es que es absurdo porque le digo vive usted en una realidad absolutamente deformada y es verdad a usted no le preocupan los controles que sean de la guardia civil si fueran de la ertzaintza tampoco porque a usted lo que no quiere

y no le preocupa que la ciudadanía vasca haya dicho no a eta en numerosas ocasiones a usted le da igual y mire ya que habla usted ha hablado

asesinada en controles de carretera por qué no condena usted ese sí un asesinato comprobado

o los dos que asesinaron en el puerto de herrera eta cuando fue ante un supuesto accidente de tráfico porque eso sí estaba comprobado lo que usted ha dicho no

si fueron actuaciones policiales desproporcionadas que actúe la justicia y que tenga responsabilidad pero haga usted lo mismo con esto que fueron también en cuestiones de tráfico

abismal entre ustedes y nosotros mire señor iturrate

y tampoco voy a decir aquí si soy española de españa vengo de españa soy no porque es que no necesito reivindicar es que yo no necesito estar reivindicándome continuamente mire yo soy española y soy vasca y no tengo ninguna pega los que intentan hacer incompatible y tienen que estar reivindicándose continuamente que son vascos

todos los días y a todas horas ni tengo que hacer victimismo todo el día como hacen ustedes que mal nos trata el gobierno que no nos da nada

mal si han conseguido la unanimidad sindical en contra de cómo llevan la ertzaintza

los que me han dicho a mí que les obligan a hacer controles un control por turno que a veces paran al mismo por la mañana y por la tarde

por la mañana y por la tarde porque va al caserío y le paran por la mañana un grupo de la ertzaintza y por la tarde el turno de la tarde eso sí eso son absolutamente proporcionales no lo entienden ni los propios ertzainas que tengan que hacer los controles pero son absolutamente proporcionados no sé si es que es usted

me niego porque no tengo capacidad suficiente para hacer esas dos comparaciones no soy como usted ha dicho no soy así de lista no será en su caso

claro que se tiene que reunir la junta de seguridad pero se tiene que reunir para lo que

que es coordinar las labores policiales no para hacer política que es lo que ustedes quieren porque la consejera y ella lo sabe tiene ofrecimiento para convocar la junta de seguridad pero solo quiere que se convoque la junta de seguridad para una cosa para que vaya un punto en el orden del día

lo único que le interesa plantear en esa junta de seguridad y la junta de seguridad es un órgano que es para la coordinación policial

a la señora consejera le interesa no porque yo lo diga porque ella lo dijo en su primera comparecencia en esta cámara el repliegue de la policía nacional y de la guardia civil

eso es lo que le interesa y si le interesa de verdad tratar en la junta de seguridad lo que tiene que tratar créame

mire señor maneiro yo realmente no había planteado una enmienda similar a la suya porque hombre hablando de controles no vamos a tener que estar reivindicando el apoyo que esta sociedad le debe

a la guardia civil y a la policía nacional porque es verdad que esto aquí se lo puso en bandeja la señora consejera y vamos cogieron la bandeja y la llevaron tan ricamente y yo creo que lo que no puede ser es que parezca que siempre tenemos que estar

después de la intervención del señor arzuaga creo que vamos es absolutamente necesario creo que no se va a votar porque se votará la enmienda de transacción pero si se vota dé

nosotros vamos a votar a favor de esa enmienda porque creo que la sociedad vasca le debe un reconocimiento a quien

defender los derechos y libertades de los vascos en este país nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea momentu honetara iritsita

gracias señora presidenta señorías el año dos mil catorce fue declarado año internacional de la agricultura familiar promovido por el foro rural mundial cuya sede está en euskadi

organizaciones civiles y del sector primario su objetivo es conseguir políticas activas a favor del desarrollo sostenible

en la unidad familiar y sensibilizar al conjunto de la sociedad civil sobre la relevancia que tiene la agricultura familiar

relacionados con el sector primario que su objetivo debe ser promover explotaciones agrarias productivas competitivas

órdenes es decir explotaciones que obtengan una renta

de los recursos naturales las explotaciones agrarias en países desarrollados se caracterizan por estar vinculadas a la unidad

en el país vasco el noventa y seis por ciento de las explotaciones el titular es una persona física y gestionan el ochenta y cinco por ciento de la superficie del territorio pero hay un dato alarmante solo el diez por ciento de las explotaciones

no nos cabe ninguna duda en el grupo popular que la sostenibilidad y el fortalecimiento de las explotaciones familiares pasa por su rejuvenecimiento

medidas que faciliten el acceso a la primera explotación a la primera actividad sin productores no hay actividad

así como desde el comité de euskadi impulsor del año internacional de la agricultura familiar solicitan y demandan a los gobiernos

organizaciones sectoriales y sociedad civil en general medidas para el reconocimiento y fortalecimiento de la agricultura familiar y que se recoge en el documento llamado impulso para la agricultura familiar en euskadi esta proposición no de ley que presentamos para su votación es el contenido de este documento que nos parece de gran valor porque

de una amplia mayoría del sector primario de euskadi decir que inicialmente desde el grupo popular intentamos que esto fuese una declaración institucional pero al no conseguir la unanimidad de los grupos de esta cámara trasladamos a proposición no de ley como digo este documento lo que décimos en esta proposición no de ley instamos al parlamento vasco o el parlamento vasco apoya las medidas para el reconocimiento y fortalecimiento de la agricultura familiar recogidas en el documento impulso para la agricultura familiar de euskadi y que son las siguientes los países deben garantizar el acceso legal prioritario a la tierra al agua al mar y demás recursos naturales

se ha de reconocer el derecho de los pueblos a producir buena parte de sus alimentos los países deben destinar en sus presupuestos cantidades suficientes para el apoyo de la agricultura familiar se debe reconocer el protagonismo de las organizaciones de agricultores como representantes de las mujeres y hombres agricultores familiares

destinadas a consensuar políticas públicas favorables

pongan en valor y reconozcan el papel de los agricultores y las agricultoras familiares para trascender de la imagen de meros receptores de la política agraria común

apoyan la mejora de la organización y capacidad de la adaptación y negociación de los hombres y mujeres agricultores en la cadena alimentaria

a favor de las personas jóvenes y de las mujeres se debe asegurar rentabilidad a la actividad agraria esta rentabilidad precisa

de facilitación del acceso a mercados de medidas específicas que la hagan atractiva para las personas jóvenes a través de servicios en el medio rural servicios sociales educativos ocio etcétera reconozcan formas de producción más sostenibles

cortos de comercialización mejoren la interlocución entre los agentes tomadores de decisiones y las organizaciones agrarias

que como digo nuestro objetivo inicial era que fuese una declaración institucional pero esperamos que cuente con una amplia mayoría

señorías muchas gracias el año internacional de la agricultura familiar ha terminado

que hagan posible el desarrollo sostenible de los sistemas

basados en la unidad familiar agrícola comunal cooperativa y pesquera un desarrollo sostenible que no es solo una apuesta por un sector

empleo está directamente ligado al principal reto de los socialistas que creemos que tenemos por delante la eficacia de la lucha contra la pobreza y el hambre y es también una apuesta por el desarrollo de un medio rural que respeta al medio ambiente

los socialistas defendemos que todos los pueblos deben tener políticas sostenibles

y que la dignidad humana en general se vea mejorada como consecuencia de una agricultura familiar más potente

se trataba de buscar con el reconocimiento del año internacional y eso es lo que debemos seguir abordando y debe incluirse en la agenda política de todos también de este gobierno porque es una oportunidad más de aprovechar

local especialmente cuando se combinan con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades

este es el olvido que el gobierno para que el sector primario

otra de estas materias en las que faltan objetivos plazos

concreciones de finalización así que este pleno puede servir para fijar estos objetivos

promover a todos los niveles políticas activas a favor del desarrollo sostenible de la agricultura familiar incluida la pesca artesanal

la legitimidad de las asociaciones agrarias campesinas y pesqueras incluyendo sus propuestas y demandas sean incluidas en las políticas

la concienciación de la sociedad y de todos los agentes sociales sobre el papel decisivo de la agricultura familiar en la producción sostenible de alimentos y en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad aclarar el reconocimiento del papel de la mujer en la agricultura familiar y contribuir al ejercicio de sus derechos específicos en esta materia propiciar políticas a favor de la juventud agraria y del empleo y rural propugnar y defender un comercio de productos alimenticios basado en reglas que fomenten la seguridad alimentaria evitando actuaciones de carácter especulativo y promoviendo la igualdad

también desde aquí este gobierno también debe promover encuentros análisis en torno al desarrollo rural

en cooperación con universidades centros de formación o de investigación incluyendo organizaciones agrarias ocupando un lugar central en todas las agencias agrícolas y de seguridad alimentaria y nutricional

son la esencia de la agricultura sostenible debemos trabajar por un futuro un apoyo en la transformación de un sector dinámico en su producción local y ayudar a fortalecer con vínculos sólidos el desarrollo en los mercados el sector agrario y alimentario vasco a pesar de avanzar por una senda competitiva siempre va a precisar

que compense su déficit estructural y dé aportación así como el propio mantenimiento de su actividad

un espacio rural vivo que tantos beneficios nos aportan por eso debemos estar concienciados nosotros y concienciar a la sociedad

modelo que tiene un rostro humano y debe ser integrador el partido socialista a mi partido

que se estén perdiendo los valores del sector primario que no solo es actividad económica que no es solo generar empleo que yo lo decía

y con la lucha contra el hambre y la pobreza y para hacerlo posible hay que dotarlo de ayudas suficientes el grupo parlamentario socialista

basados en la unidad familiar por eso pedimos al gobierno vasco más ayudas a las explotaciones más esfuerzo con los jóvenes

de esta actividad facilitando el acceso a mercados

esforzándose en garantizar todo tipo de servicios en el medio rural servicios sociales educativos ocio entre otros

esto es lo que proponemos y para eso debe servir este debate de hoy

no quede en el pasado y siga teniendo un futuro seguiremos el grupo socialista trabajando

a iniciativas y control de este gobierno para que trabaje

y fomentar el impulso de la agricultura familiar y que se haga efectivo el grupo socialista presentó en su momento una enmienda para

agricultura familiar no hemos tenido oportunidad de acordar o de trabajar con el partido proponente

que debemos tener o trabajar para obtener un acuerdo institucional para el avance y el refuerzo de la agricultura familiar tan importante
en el sector primario muchas gracias presidenta eskerrik asko

hitzez hitz onartzen direla ondorengo hauek el derecho de los pueblos a producir una buena parte de sus alimentos edo se reconozcan